proposición no de ley que pretende traer

que están viviendo en este momento las escuelas infantiles en nuestra comunidad como todos ustedes saben las escuelas infantiles desde siempre han tenido un doble objetivo la atención educativa integral a los niños y niñas

además la atención social a las familias en el ámbito de la conciliación laboral y familiar es esa etapa

una etapa fundamental en la que se inicia la adquisición y el desarrollo del lenguaje en la que se desarrolla la atención se propicia

logros que serán y que formaran parte del núcleo de la estructura

y establecerán interacciones sociales y conformaran en definitiva la personalidad futura de los niños y niñas en euskadi

mucha importancia a la incorporación de ese ciclo como algo que se tenía que incorporar a la oferta educativa de nuestro país

la propuesta del gobierno vasco supone a nuestro juicio

los presupuestos destinados a la red pública al consorcio haurreskolak es verdad que se han ido reduciendo las partidas destinadas

a las aulas de uno de dos años que

de titularidad privada de iniciativa social que han querido también incorporar porque es además existe demanda esas aulas de uno dos años a sus centros educativos pero es verdad que esa propuesta del gobierno la que vimos la que

traen en la prorroga presupuestaria supone un duro golpe a la vía de implantación de ese ciclo cero tres

dificulta y prácticamente anula la posibilidad de abrir aulas de uno dos años en esos centros concertados estamos hablando de que

mientras se han ido incrementando del orden de un veinte por ciento creo que un veintitrés por ciento la financiación

la red al consorcio haurreskolak el año pasado si hacemos una perspectiva

vemos como la financiación del consorcio haurreskolak ha aumentado hasta superar los cuarenta millónes de euros

ese mismo periodo de años a la red concertada

y estamos hablando de los mismos alumnos cuarenta millónes para haurreskolak

cuarenta millónes para uno dieciocho millónes para otros cuando estamos hablando de que la red concertada está ofertando aulas para prácticamente el doble de alumnos

que el consorcio haurreskolak esa reducción por tanto

pues ha producido de verdad alarma en el propio sector plantea

supone un riesgo para la continuidad de muchos centros no todos los centros de la red concertada viven

enormes dificultades financieras esta reducción se añade a una reducción continua de los últimos años

teniendo en cuenta esa gran diferencia entre los alumnos de una red y de otra el hecho de que haurreskolak además reciba anualmente apoyo de muchos ayuntamientos en determinados centros supone a nuestro juicio

que supone de facto una falta de equidad antes hablábamos de equidad en el sistema educativo hablábamos de equidad

lo que estamos haciendo es abordar aquí también una falta de equidad

financiación del ciclo cero tres de la financiación de las escuelas infantiles un agravio comparativo hacia esos alumnos porque

para la continuidad para la propia previvencia de muchos centros concertados porque

un aumento significativo de la cuota nos lleva además a un modelo insostenible nosotros hemos querido traer

conozca que hoy esto es un clamor del propio sector educativo que la red concertada está viviendo momentos complicados y que necesitamos

es de justicia que el gobierno se comprometa se comprometa a mantener en el presupuesto prorrogado para el dos mil trece las partidas correspondientes a escuelas infantiles privadas al ciclo cero tres

con la misma dotación presupuestaria con que se contaban en el ejercicio dos mil doce

y de acuerdo con el grupo socialista que hemos llegado a una enmienda de transacción además de exigir al gobierno instarle a que mantenga

en la prórroga de este año para las escuelas infantiles además no nos olvidamos de la red pública y no nos queremos olvidar

también instamos al gobierno a seguir impulsando el concorcio haurreskolak incorporando porque es una demanda y además

a aquellas escuelas infantiles de titularidad municipal que quieran hacer el traspaso a este consorcio es verdad que esto lleva tiempo y además exige esfuerzo presupuestario pero nosotros creemos que tiene que haber también un compromiso que puede ir en paralelo compromiso

para ir permitiendo que otras escuelas infantiles que otros municipios se puedan incorporar a ese consorcio haurreskolak fortalecer esa oferta pública en el cero tres pero garantizar de una manera efectiva la continuidad

garantizar las aulas de uno y dos años en los centros concertados de nuestra comunidad creemos que es una tarea y un compromiso que debemos adquirir

señora consejera emocionalmente puedo ser comprensiva con usted en el sentido de que usted tiene

pocos recursos pero realmente no puedo como miembro de la oposición aceptar que la reducción

hacer algunas reducciones pero no tan sustantivas como la suya yo dejé dos mil doce dos mil trece señor oyarzabal en veintiséis millónes seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos ocho euros para no vamos a decir concertada porque ahí no hay concertación

del sistema educativo fue un sistema educativo que era realmente complementario en dos redes pública y concertada

nosotros trabajamos tal y como ha dicho el señor oyarzabal impulsando más haurreskolak que lo que fue

a la línea más privada así durante nuestra época

más en haurreskolak trescientos noventa y cinco nuevos puestos de trabajo fueron creados creamos cuarenta y tres centros nuevos

y seguimos pensando que la educación temprana es un factor clarísimo de éxito escolar y además es un factor de competitividad y es nuestra ventaja competitiva europa

los compromisos dos mil veinte tiene como objetivo llegar

años que tenemos conseguido ese objetivo pleno

tenemos conseguido en el cero dos casi un cuarenta por ciento de escolarización esto obviamente es una ventaja muy importante sobre todo para la sociedad

es importantísimo para la calidad de la educación que

temprana edad puedan acceder a un sistema educativo asistencial yo comprendo los problemas que puede tener el gobierno pero realmente tenemos que impulsar entre todos y entre todas esta política por lo tanto hemos podido llegar a un acuerdo en torno a estas dos cuestiones en el punto uno el parlamento insta al gobierno

prorrogado para dos mil trece las partidas correspondientes de ayudas a escuelas infantiles privadas cero tres años con los mismos recursos

es decir los veintiséis millónes y pico que hemos comentado en el punto dos que hemos tenido una corrección con el fin de dar entrada a bildu porque interesa realmente que esto sea una política y además en la práctica lo es impulsado por la mayoría de esta cámara hemos

asimismo insta al gobierno vasco a seguir impulsando el consorcio haurreskolak con la financiación necesaria para garantizar una oferta pública equitativa suficiente y de calidad incorporando también en el mismo

en esa oferta aquellas escuelas infantiles municipales que quieran hacer el traspaso a este consorcio sabemos que las hay conocemos a muchos alcaldes que están a la cola

en haurreskola siempre respetando los derechos de las

en las escuelas infantiles municipales que merecen todo nuestro respeto y desde luego consideración laboral yo al gobierno le digo que aproveche ciertamente el acuerdo

en ese acuerdo político claramente se habla de garantizar

del presupuesto voy a decir dos mil doce para el sostenimiento y funcionamiento de los servicios este es un servicio esto es política real esto no es una inversión en infraestructuras por lo tanto yo creo que siendo

educativo en su conjunto y teniendo como tenemos un acuerdo real porque es real porque así ha venido siendo la política en este país

exclusivamente dinerario yo creo que debe hacer un esfuerzo incorporar aquellas partidas yo sé que está iniciando algún movimiento a ese respecto para incorporar aquellas partidas que son necesarias para seguir esta política de tanta importancia y que tal ventaja competitiva
da al sistema educativo vasco con respecto a los otros nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea

señora celaá no me extraña que usted esté emocionalmente con la consejera

le tocó hacer algunas reducciones pero es que lo que usted no ha dicho es que usted tenía la ventaja de tener

y algunas reducciones pues ya daré algunos datos sobre eso no estoy nada de acuerdo en lo que ha dicho pero estoy emocionalmente con usted también

a favor de la enmienda de transacción si es que finalmente la definitiva es la que nos han repartido creo que sí que efectivamente la definitiva en caso de que sea así votaremos a favor
de la misma gracias eskerrik asko maneiro jauna

presidenta no es la misma que hemos repartido se ha modificado el segundo párrafo y lo van a repartir ahora mismo pero viene a decir lo mismo señor maneiro no se preocupe usted que hace muy bien en votar a favor porque

el primero venía a instar al gobierno a mantener presente ejercicio la dotación presupuestaria para los programas de subvención

escuelas infantiles privadas y la segunda tratábamos de reforzar el consorcio

en el cero tres y el consorcio haurreskolak en este caso posibilitando el traspaso por parte de los municipios que así lo quieran al consorcio haurreskolak tal y como lo ha leído en la tribuna la señora celaá

las condiciones de calidad y las condiciones de los trabajadores eso es lo que hemos incorporado en el segundo punto es verdad que me ha bailado uno de los tantos por ciento pero yo

es verdad que yo traía esta proposición no de ley

a esta cámara a la preocupación sobre como lo está viviendo en este momento el sector educativo

con una apuesta que también han hecho quieren hacer y quieren seguir haciendo para abrir aulas de uno y dos años los centros concertados han visto como para el ciclo cero tres la tabla que nos han facilitado a todos los grupos

muy importante conocer los datos año dos mil nueve consorcio haurreskolak recibía de los presupuestos de la comunidad autónoma treinta y cinco millónes seiscientos mil euros y la red concertada treinta y dos millónes trescientos mil parece que había ahí un equilibrio

pero ya para el año dos mil diez el consorcio haurreskolak aumenta hasta los treinta y siete millónes y medio y la red concertada se mantiene en los treinta y dos millónes cuatrocientos mil en el dos mil once

y la red concertada ya baja a veintinueve millónes quinientos mil en el dos mil doce

recibe una nueva inyección que aumenta su presupuesto a los cuarenta y cinco millónes de euros mientras a la red concertada se le vuelve a meter un tijeretazo que la deja en veintiocho millónes de euros y en el año dos mil trece nos encontramos que lo que partía en el dos mil nueve

en la red pública y concertada tenemos que el consorcio haurreskolak recibe cuarenta millónes y medio y la red concertada con el doble de alumnos recibe solo dieciocho

estamos hablando de veintitrés para este curso pero qué estaba cuál es la previsión en las partidas para la escuela privada para el curso siguiente porque el curso estamos en este ejercicio estábamos en el curso dos mil trece dos mil catorce

toca mitad de un curso y mitad de otro y la red concertada ve que va a vivir un momento sino hay un esfuerzo concreto del gobierno

al menos del año anterior y se sigue con esta tónica de rebaja presupuestaria muchos centros se van a ver abocados al cierre

en el ciclo cero tres aumentos significativos en la cuota de matrícula en la cuota mensual de esos centros creo que en este momento

que los módulos de concertación están siendo bajos se esta siendo cicatero con el servicio que esta prestando de calidad la red concertada y creo que en este caso además de fortalecer la oferta pública de calidad tenemos que garantizar

por abrir aulas de un año y dos años en los centros concertados en el conjunto de nuestra comunidad

para afirmar lo que ha dicho el señor oyarzabal efectivamente nosotros con toda claridad y eso no lo hemos ocultado en ningún momento

y por esa razón las plazas se incrementaron en un treinta y dos por ciento

y el presupuesto se incrementó en un veintinueve por ciento efectivamente nuestra política fue clara a ese respecto pero no es verdad que haya más gente en la no pública que en la pública en esta primera etapa de educación infantil por tanto

y espero que se siga sinceramente yo creo que la educación los poderes públicos tienen una obligación que es con respecto a su oferta pública

no negando eso en absoluto sí que observo que realmente el porcentaje y no necesito mucha experiencia en matemáticas al respecto el porcentaje que se deriva del doce trece es decir del once doce doce trece trece catorce el doce trece al trece catorce por lo menos en lo que nosotros hemos podido llegar a saber

para la no pública del once coma treinta y seis un porcentaje que nosotros en toda nuestra línea nunca aplicamos y es por esto

aún ejerciendo una política que yo deseo que sea favorable a la pública porque la pública a de ser el referente pues yo creo que eso hay que transcribir itinerarios

a todas las personas que puedan hacer una demanda en el cero dos nada más y muchas gracias eskerrik asko

esango didazu zuk que no es una rebaja de más del once por ciento dena den esadazu nondik kendu behar dugun

baina erantzukizunez jokatu behar dugu el núcleo central es la oferta pública pero para nosotros la privada sigue siendo un servicio complementario y fundamental y nosotros

indecente no consideramos indecente subvencionar escuelas infantiles privadas como hace su grupo en el ayuntamiento de madrid los socialistas madrileños consideran indecente subvencionar escuelas infantiles privadas

por eso y porque la actual crisis económica en que nos encontramos nos hace tener menos recursos económicos y nos hace tener más necesidades sociales y eso todo ello no nos olvidemos dentro de un modelo de gobernanza europeo exigente con la deuda y el déficit por tanto hay que ser más realistas hay que ser más rigurosos porque la salida de la crisis va a ser lenta y prolongada en el tiempo

aurkitzea eta azalaraztea ahalbidetzen duena si estamos de acuerdo en que el fraude fiscal es una lacra social y supone desigualdades si estamos de acuerdo en que tenemos una obligación un compromiso desde las administraciones públicas de perseguir el fraude fiscal porque hay demasiado dinero en manos de personas que lo ocultan a los ojos de las haciendas públicas y creemos que hay que saber dónde está ese dinero

si queremos que esos impuestos que no se están recaudando se recauden y así podamos contar con mayores recursos para financiar la educación la sanidad o los servicios sociales por qué por qué a la hora de poner en marcha las herramientas para ello

herramientas que desde el mes de mayo puso sobre la mesa la diputación de gipuzkoa y por qué algunos empiezan a buscar excusas para no hacerlo cuál es el miedo

que nos dé la oportunidad de hablar de un asunto del que no hemos hablado en los últimos

solo unas veinticinco veces y por lo tanto este asunto novedoso del cual repito que me alegro tener la oportunidad

tres grupos que todos estamos de acuerdo en que haya convenios entre las administraciones públicas

de que las tres diputaciones se pueden ampliar los convenios a navarra y a la agencia tributaria pero parece que tenemos escaso éxito

yo tema tan novedoso después del pleno monográfico de unas veinte propuestas o proposiciones no sé cuántas en la mesa no se han admitido por reiterativas

pensamos que los convenios de todas las administraciones tributarias se deben hacer las que no los tengan hechas
y por lo tanto poco más tenemos que añadir eskerrik asko damborenea jauna mistoa

sí gracias presidenta nosotros en este punto hemos presentado una enmienda de totalidad que

lo que llevamos defendiendo se puede decir que históricamente en este parlamento en relación con lo que debe hacerse para luchar más y mejor contra

históricas por un lado la puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y por otro lado que en este plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal se incluya

entre todas las administraciones tributarias y la utilización de todos los mecanismos de interconexión de datos que sean necesarios para combatir el fraude fiscal

medidas tan concretas como estas han sido rechazadas

al menos durante la pasada legislatura y parece que ahora lo fundamental de lo que nosotros proponíamos se recoge en esa acertada enmienda de transacción que por fin ustedes

ciertamente ya se votó hace exactamente no sé si un mes o una cosa así

un punto de las propuestas de resolución planteadas

apoyó y sin embargo en este caso sorprendentemente no han tenido ustedes a bien ofrecer la posibilidad a upyd de firmar esta transaccional que nosotros compartimos una cosa es ser crítico con el pacto fiscal que ustedes han firmado

es que ustedes reconozcan que nosotros estamos de acuerdo con esto que ustedes proponen y por eso votaremos a favor de esa enmienda de transacción

años atrás esto es lo que nosotros le planteamos en las diferentes reuniones que tuvimos con el partido nacionalista vasco

fiscal firmado entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco que nosotros compartimos y esto es lo que se votó y se aprobó en este parlamento durante el debate monográfico sobre fiscalidad nosotros votamos a favor de esta propuesta de resolución

esta enmienda de transacción a ustedes se les ha olvidado ofrecernos firmar esta enmienda de transacción porque quizás consideran que ese pacto fiscal que ustedes han firmado

en su globalidad nosotros no lo asumimos en su globalidad por las razones que pudimos dar en ese debate monográfico pero también dijimos que algunos de los puntos planteados en ese pacto fiscal inicial entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

de hecho si no recuerdo mal de las treinta y dos propuestas de resolución que ustedes presentaron en ese debate monográfico nosotros no tuvimos ningún problema en apoyar

hoy volveremos a votar a favor de esta enmienda de transacción

ojalá este acuerdo hubiera sido posible antes porque además había mayoría suficiente para poder llevarlo a cabo no se hizo en fin nunca es tarde o quizás sí

se pueda poner en práctica cuanto antes a nosotros nos parece correcto seguramente

o no recoge todo lo necesario para luchar más contra el fraude fiscal

un paso adelante importante votaremos a favor gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jauna

presidenta señorías yo creo que para

que no haya tantas sorpresas como la mencionada por el señor damborenea

habría que situar esta iniciativa en la fecha en la que se produjo que es el veintinueve de mayo en ese momento es cierto que a pesar de que haya habido distintos

generales sobre política fiscal como en diversas iniciativas entre otras una del señor maneiro se había hablado de la interconexión

para la lucha contra el fraude fiscal es cierto que se hicieron muchos intentos y que fue el veintiséis de septiembre en ese pleno de política fiscal

por nacionalistas y socialistas que a su vez provenía del acuerdo alcanzado para la sostenibilidad la modernización la promoción

del país vasco entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de entonces de cuando esta iniciativa se presentó

una serie de sucesos que han dejado desvirtuada aquella iniciativa por ya conseguida

deseaba porque en ese acuerdo de lucha contra el fraude fiscal que está en el acuerdo que hemos suscrito se coge como

de convenios entre administraciones por parte de la diputación foral de gipuzkoa de esta manera esta mañana así se lo hemos planteado a la señora

porque entendíamos que no había ninguna diferencia entre lo que ella planteaba y lo que

un acto nacido del cielo

esto y que además es mucho más amplio porque como han podido ver este es un apartado de la resolución sexta que se presentó pero en ese paquete de medidas contra el fraude fiscal había otra muchas medidas algunas relacionadas directamente con lo que es el fraude pero otras relacionadas

de la legislación en materia fiscal para que no se pueda producir en fin

y de iniciativas por eso pensando que estábamos en sintonía y después de las manifestaciones que se han hecho aquí más la manifestación

hay la oportunidad de hacer unanimidad en un aspecto en el que estamos todos de acuerdo salvo que uno esté debatiendo o peleando por las fechas

corresponde al veintinueve de mayo o corresponde al veintiséis de septiembre que es cuando se aprueba el pleno de política fiscal por lo tanto

resuelto que además es un asunto que tiene el consenso de todo el mundo y espero que no haya ningún problema de protagonismo

para que podamos estar todos de acuerdo ahora que hasta el señor maneiro quiere firmar usted ha empezado a decir una cosa ha dicho

vamos a decirlo entero nunca es tarde si la dicha es buena

tendrán ningún problema a que usted firme no se preocupe que se haya repartido tampoco es un problema de celulosa eso se arregla usted estampa la firma

el detalle de dirigirme a usted y de haberle solicitado

sí estaba en la intención aunque no en la ejecución como se ha podido observar pero nunca es tarde luego lo podemos resolver de esta manera en fin espero que podamos también contar con el apoyo

como he dicho no hay ninguna diferencia entre lo que ellos plantean

me alegra ver que todo el mundo está de acuerdo en que la interconexión el intercambio de información en materia fiscal

una lucha contra el fraude eficaz y ágil es una vía a seguir pero es que por muy repetitivo que le resulte el tema al señor damborenea que ya sabía yo que me iba a decir eso porque

en marzo el representante del pnv haciendo mención a palabras del señor damborenea dijo la interconexión de base de datos

inspecciones etcétera son recurrentes y son temas que como anteriormente debatiendo el señor damborenea ya se están realizando si ya se estaban realizando dónde está el descubrimiento de este acuerdo no lo entiendo porque en marzo según ustedes se estaba realizando pero ustedes no querían firmar ninguna propuesta interconexión en tiempo real me alegro que unos meses más tarde hayan venido hacia donde

en tiempo real era un medio y es un medio eficaz

me alegro bienvenidos al barco respecto a la enmienda presentada finalmente por los tres grupos firmantes del acuerdo fiscal

vasco partido socialista de euskadi y partido popular bien podemos estar de acuerdo en el contenido pero que no se olviden que ustedes han puesto se reafirman o se no me acuerdo exactamente de la palabra porque en lo dicho en el monográfico

nosotros no nos posicionamos sobre este tema en el monográfico porque ustedes decidieron que había que votar todo a la vez y por lo tanto en aquellos temas

una vía porque habían llegado a un camino que podría tratarse

por lo tanto aquello quedó como quedó y ustedes lo saben porque si ahora nos vuelven a traer una propuesta de resolución

a la proposición inicial una propuesta de resolución que ustedes ya tienen aprobada

sobre la propuesta inicial se van a otro tema de un acuerdo que han firmado ustedes a posteriori y no

sobre el que se está trabajando y sobre el que todos sabemos que hay en ciertos ámbitos que no se quiere avanzar o por lo menos ahora no se ha querido avanzar

empezamos a dar vueltas y no se acaba de avanzar y ese tema está encima de la mesa

en el papel se solucionará porque todos creemos que realmente es el camino y nosotros seguimos estando en el mismo sitio y lo mismo que proponíamos esto tenemos otras propuestas en política fiscal que ya sé que ya se han tratado pero es que volvemos a lo mismo se trataron como se trataron

lo malo no es que lo hayamos debatido unas cuantas veces con anterioridad

en siguientes periodos de sesiones o durante este mismo periodo de sesiones

que es que todos los interesados en hablar de esto en esta cámara yo no veo que lo planteen donde tendrían que plantearlo que serían en las juntas generales en el congreso de los diputados es decir donde se les puede obligar a los que desde aquí se les dice que tienen que llegar a convenios en fin

pero no somos quienes para obligarles a firmar ningún convenio o sea

o en el congreso de los diputados si alguien tiene algún interés de firmar algún convenio con la agencia tributaria señor maneiro lamento profundamente que no le hayan pasado la firma la propuesta porque nos habríamos ahorrado ocho minutos y habríamos terminado un poco antes y señor prieto yo decirle que

como hemos planteado nosotros siempre dentro del ejercicio de las respectivas competencias de cada administración

es decir sobre los sujetos pasivos dependientes de esa administración tributaria y no de otras cosas y

todas las administraciones tributarias y usted lo sabe y usted lo sabe porque llevan gestionando la diputación de gipuzkoa hace ya

todas vuelcan los datos y lo sabe periódicamente de todos los contribuyentes desde hace muchos años

y sabe por qué porque las leyes fiscales exigen la colaboración de todas las administraciones públicas en esta materia entonces sin necesidad de hacer convenios

y se produce que además queremos hacer convenios nos parece fenomenal

lo que digan los inspectores de hacienda lo que los inspectores de hacienda consideren cada vez que sea necesario para que su trabajo sea más efectivo pero no porque nos lo diga alguien que en fin

hasta el momento a la fecha muy interesado en preguntar qué necesitan los inspectores de hacienda si es que necesitan algo más de lo que ya tenían
para mejorar su labor nada más y muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

sí gracias presidenta de manera muy clara pero también de manera muy breve hemos conseguido por fin que el partido nacionalista vasco y el partido popular firmen una transaccional que durante años se han negado a firmar

y algún otro grupo también lo hemos venido defendiendo durante los últimos cuatro o cinco años y ustedes han venido repitiendo que no era en absoluto necesario hacer nada porque la lucha contra el fraude fiscal

a mejorar el intercambio de información a la interconexión informática etcétera etcétera etcétera porque decían permanentemente que la lucha contra el fraude fiscal

ustedes han recogido en esta enmienda transaccional planteamientos que nosotros venimos defendiendo durante cuatro años y medio y por esto era por lo que yo quería no solamente votar esta enmienda de transacción sino también firmarla lo importante posiblemente era votarla ciertamente ya se votó el pasado día veintiséis de septiembre y nosotros lo apoyamos

y ahí está finalmente nuestra firma pero insisto esto es lo que hemos venido defendiendo durante cuatro años y medio y ustedes permanentemente se han

bienvenido por lo tanto al club de los que pensamos que se podía y todavía se puede por cierto hacer mucho más para luchar más y mejor contra el fraude fiscal

los trabajos el oasis de la memoria memoria histórica y violaciones de derechos humanos en el sáhara occidental coordinados por carlos martín beristain y eloisa gonzález hidalgo y meheris

fosas comunes y primeros desaparecidos saharauis identificados coordinado por

recogen en dos fases diferentes de análisis riguroso y científico

fruto del análisis de cientos de historias compartidas testimonios reales

dituela los informes están avalados entre otros por instituciones

hegoa o la universidad del país vasco por todo ello el parlamento vasco

por los informes científicos referidos se compromete a trabajar firmemente en la defensa de la república árabe saharaui democrática a la vez que declara lo siguiente bat

exige al reino de marruecos el escrupuloso respeto de los derechos humanos

el cese de la represión y la inmediata liberación de los presos políticos saharauis hiru era berean espainiako gobernuari eta europar batasunari eskatzen die